ha quedado vieja y desfasada seis meses en el cajón y como no tenían nada más a mano para traer aquí sobre cataluña han sacado

este debate creemos que la propuesta parte de un supuesto radicalmente falso piden que esta cámara y lo he visto en la enmienda transaccional firmada con el pnv tache de proceso democrático la resolución de soberanía realizada por el parlament de cataluña y proclama el derecho de los pueblos a decidir su futuro

es demasiado fácil demasiado simple tener la mayoría incluso la unanimidad a veces no significa que sea el único requisito para que una decisión tenga el marchamo

como definir el sujeto que decide o que la decisión se produzca en el ámbito de nuestras competencias este parlamento puede decidir muchas cosas pero no puede ir por poner un ejemplo extremo a declarar la guerra a japón o derogar un tratado de la unión europea no tenemos competencia

las aspiraciones ideológicas no son derechos fundamentales indiscutibles en un sistema democrático uno no puede decidir todo lo que le apetezca y como ha señalado hace poco el escritor javier cercas ciudadano catalán por cierto por muy libre y soberano que te sientas no puedes decidir saltarte un stop porque te dé la gana o no pagar los impuestos que te corresponden si no

por la diputación de gipuzkoa si reconoce la legitimidad democrática de los ciudadanos y ciudadanas guipuzcoanos a no pagar por ejemplo los peajes de la autopista a ver qué le contesta el señor garitano o la señora franco sobre esa cuestión

político en cataluña claro que sí claro que hay que darle una respuesta claro que hay una parte de ciudadanos también en euskadi que no están conformes con el marco de relación con el conjunto de españa pero ese problema no lo solucionamos forzando las normas saltándolas o jugando con las palabras para confundir al ciudadano si uno quiere un referéndum sobre la independencia no puede ni debe refugiarse en una ley de consultas autonómica prevista para aquello sobre lo que sí pueden pronunciarse los ciudadanos catalanes como si fuera igual consultar sobre lo legal

doble pregunta una fórmula que podría conducir a que algo tan transcendental

de los votos pero lo peor no es eso lo verdaderamente cuestionable es que a la ciudadanía catalana se le ha vendido el supuesto derecho a ser consultado

como algo inocuo y natural sin explicarle con claridad las consecuencias que eso entraña para su vida hablemos claro el llamado derecho a decidir ustedes es para lo que es para decidir la independencia no para decidir si se instala una planta de energía en un pueblo

un referéndum a sí o no o así sí como lo plantean en el parlament de cataluña es un mal método para determinar el futuro de una sociedad si no hay un consenso previo y mucho menos lo es para medir cuál es realmente la opinión consciente e informada de la ciudadanía sobre un asunto tan complejo

o el mantenimiento de relaciones tejidas durante siglos y generaciones entre una comunidad y el conjunto del estado al que pertenece estamos hablando de lazos afectivos

de esfuerzos compartidos pero también de economía de nivel de vida de pensiones de moneda de pertenencia a la unión europea de muchas cosas de las que se ha debatido con transparencia en escocia

el proyecto de mi partido para euskadi no pasa por el derecho a decidir tal como ustedes pretenden practicarlo sino por seguir viviendo decidiendo y progresando juntos pasa por perfeccionar profundizar el marco y mejorar el marco de convivencia que acordamos hace treinta y cinco años con la constitución y el estatuto perfeccionándolo hacía fuera

y también igualmente mejorándolo y haciéndolo mucho más eficiente hacía dentro

porque creemos que es la que mejor responde a los intereses y al pluralismo de la sociedad vasca porque consideramos que no nos ha ido mal hasta ahora y porque creemos que siguiendo juntos nos puede ir todavía mejor por eso respaldaremos nuestra enmienda

los principios que venimos defendiendo que ofrece vías de solución que habla de futuro

y votaremos en contra del resto porque parten de supuestos falsos porque esconden las verdaderas voluntades y siguen bailando entre dos aguas o porque simplemente se quedan en confirmar
lo que hay sin ofrecer cauces para dar salida a los problemas reales eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea

sí gracias presidenta puesto que hablamos de cataluña

mostrando nuestra solidaridad con los miles de catalanes víctimas de los recortes sociales impulsados por su propio gobierno autonómico

la precariedad laboral la pobreza la desigualdad y los desahucios nuestra solidaridad con los miles millónes de catalanes olvidados y abandonados por un gobierno autonómico en manos de un partido político afectado y conviene recordarlo por gravísimos casos de corrupción política

no se han depurado y nuestra solidaridad en fin con los miles y millónes de catalanes víctimas de un gobierno que lejos de resolver sus problemas reales los lleva por la senda de la confrontación la división y el enfrentamiento

nuestros conciudadanos españoles que habitan en cataluña sean nacionalistas independentistas o ciudadanos a secas en definitiva y por resumir que su gobierno no solo se muestra incapaz de resolver reales sino que les crea problemas añadidos nuevos y que ha decidido llevarlos a un callejón sin salida provocando enfrentamiento y división

qué sentido tiene la independencia de un pequeño territorio en la europa que queremos construir ninguno no tiene ningún sentido precisamente tal propuesta

profundamente antidemocrática y claramente ilegal sino absurda

y en la europa de ciudadanos que queremos construir por lo tanto es una propuesta antidemocrática ilegal absurda

reaccionaría porque no hay nada más reaccionario que levantar fronteras entre unos ciudadanos y otros nosotros preferimos seguir trabajando

una europa de ciudadanos libres e iguales una europa sin muros ni fronteras ni barreras interiores

y más democráticas de las que hoy disponemos y desde luego una europa más disponible más dispuesta y más preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y más capaz de mejorar

ser un pequeño estado país o territorio tiene muchas más desventajas que ventajas en fin salvo las ventajas sentimentales de algunos

merece la pena entrar de hecho es a eso a lo que nosotros aspiramos a vivir en una europa unida y diversa donde quepan los sentimientos de todos

y las mismas obligaciones y desde luego más social más igualitaria y más solidaria por esto es por lo que nosotros luchamos para mejorar por lo tanto

más allá de las ansias absolutamente absurdas del ideario habitual de todos los nacionalismos por lo tanto en fin más capaz

no les he convencido aún de que su pretensión es absurda cosa que por otro lado es materialmente imposible nos queda recordar la legalidad vigente la vigencia de la constitución española y el estado de derecho y que el modelo territorial del estado entre todos los ciudadanos españoles y que la ciudadanía no se puede fraccionar y que la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles

en ninguna constitución democrática del mundo y que fuera de la ley no hay democracia y que los ciudadanos podemos decidir efectivamente pero en el marco de nuestras competencias es por esto por lo que nosotros hemos querido presentar esta enmienda de totalidad que recoge

en relación a esta cuestión una enmienda criticada ahora mismo por la señora mendia pero que sin embargo

en el congreso de los diputados firmada y votada por el partido popular el partido socialista obrero español y upyd cuando se debatió este asunto en ese congreso hace escasos meses esa misma enmienda es la que nosotros hemos querido

y muy necesario defender lo mismo en el congreso de los diputados o en las diferentes cámaras autonómicas por lo tanto esta enmienda que nosotros presentamos es la misma enmienda que se aprobó en el congreso de los diputados y que fue firmada por el partido popular y por el partido socialista a pesar de que hoy la señora mendia la critica aunque nadie me lo ha pedido haré una reflexión sobre la llamada tercera vía que algunos plantean para solucionar las pulsiones nacionalistas es seguro que algunos la plantean con toda la buena voluntad pero en mi opinión no solucionaría ni uno solo de los problemas que existen a día de hoy en españa los nacionalistas insaciables ya han dicho que no les vale y además y seguramente más importante si se optara por una supuesta solución tipo pacto fiscal o concierto económico para cataluña tal supuesta solución

la inviabilidad del propio estado y por lo tanto además de injusta imposible de llevar a la práctica lo que el país necesita

lo que españa necesita y también europa es más igualdad más cohesión y más solidaridad menos barreras por lo tanto en lugar de más muros que dividen a ciudadanos que pretendemos vivir juntos estos principios la igualdad la cohesión la solidaridad nos benefician a todos también a los ciudadanos nacionalistas lo mejor

es no ceder un ápice ante las reivindicaciones nacionalistas no solamente porque son insaciables sino porque ceder ante sus pretensiones perjudicaría gravemente el interés general de los ciudadanos y pensamos que bastante se ha cedido ya durante demasiados años nosotros defendemos una reforma de la constitución española lo llevamos defendiendo varios años la constitución española como todas las leyes pueden cambiarse y nosotros queremos una reforma de la constitución española pero no para acomodar

sino para modernizar el país y defender la igualdad de todos los ciudadanos y el interés general en concreto para ir hacia un estado federal simétrico

para acabar con las duplicidades y las ineficiencias existentes en nuestro estado autonómico para modernizarnos internamente para garantizar

los problemas reales de los ciudadanos y para seguir avanzando en la construcción de una europa la europa de los ciudadanos más cohesionada y potente

y transparente a través también del traslado de más competencias a las instituciones europeas a pesar de que el camino para alcanzar estos objetivos está amenazado por los nacionalismos pequeños y por los nacionalismos grandes de estado que dificultan la construcción nosotros somos optimistas y abogamos por ello a pesar de las dificultades ciertamente graves que vive a día de hoy europa la senda por lo tanto tiene que ser esa más igualdad más cohesión menos menos fronteras interiores poder por lo tanto seguir viviendo juntos y ocuparnos realmente de los problemas reales de los ciudadanos especialmente

de los casos de corrupción o de los recortes sociales que unos gobiernos y otros han venido impulsando en fin por todo esto evidentemente

en contra de la iniciativa original y votaremos en contra de la transaccional que los grupos nacionalistas han terminado firmando gracias eskerrik asko maneiro jauna

creo que vivimos tiempos ciertamente confusos en los que

suelen tener la tentación de utilizar frases gruesas para calificar con cierta facilidad

torticera rotundidad las actitudes y las voluntades de unos y de otros generalmente estos tiempos confusos son perfectamente propicios para que

determinados discursos se arroguen la representación o

y rotundos decía el señor egibar que este debate se ha producido en esta cámara en numerosas ocasiones y que

que todos sabemos y por lo tanto los argumentos se repiten suenan a manidos

los verdaderos problemas de los ciudadanos son el empleo son las políticas sociales son la mejora de la economía y eso es cierto

volviendo a escuchar los mismos argumentos una y otra vez sino que uno

los mismos argumentos atrincherados que no nos llevan a ningún sitio y este debate que hoy nos plantea el partido nacionalista vasco y eh bildu con su acuerdo

es verdad que se ha planteado históricamente en esta cámara y en otras muchas pero en esta cámara

sorprendentemente confusas y pretendidamente confusas por un lado se utilizan argumentos jurídicos en algunas ocasiones por otro se mezclan

pero la mayoría de las veces desde la utilización extenuante y torticera de eufemismos en ocasiones desde el reconocimiento claro de intenciones pero la mayoría de las veces desde la ocultación interesada de los mismos hoy supuestamente venimos a hablar nada más y nada menos que de una resolución del tribunal constitucional pero se mezcla con cataluña se mezcla con escocia se mezcla con euskadi con el derecho a decidir etcétera etcétera y así sin solución de continuidad y así no hay manera de acuerdo la realidad es que hay un hecho incuestionable vivimos en un estado democrático

que no hay ningún derecho ilimitado ni absoluto porque la democracia y el respeto al derecho son conceptos indisolubles en cualquier democracia moderna y esto no es una opinión esto que acabo de decir no es una opinión sino es uno de los principios más básicos del derecho constitucional

también como todas las constituciones modernas que hay en el mundo y en esto no somos ninguna singularidad protege la soberanía nacional como no puede ser de otra manera

por eso no permite que los cambios de gobierno o los vaivenes de mayorías puedan repercutir en ellos también prohíbe

que los titulares de esos derechos puedan renunciar a ellos por ejemplo que se suprima el derecho de huelga ni aunque los trabajadores lo quieran

aunque haya una mayoría parlamentaria que así lo pida o que

no se permite cualquier cosa el ordenamiento constitucional no lo permite y la tarea

en la iniciativa de origen es entre otras la de enjuiciar la constitucionalidad de las leyes para estar seguros de que ninguna ley lesiona los valores los principios y los derechos recogidos en la constitución y gracias a todo eso gracias a todo eso como en cualquier otra democracia

gracias a todo eso todo el mundo sabe de antemano que puede confiar en que ningún gobierno o ningún parlamento sean sus principios políticos los que sean

a lo mejor sino porque afortunadamente no podrá hacerlo de la manera que le de la gana

exactamente sobre esto es sobre lo que se ha pronunciado el tribunal constitucional y sobre esto exactamente sobre esto su pronunciamiento ha sido impecable

lo que el partido nacionalista vasco y eh bildu de la mano rechazan hoy algo verdaderamente sorprendente

constitucionales una trampa dialéctica y hay que reconocer tenemos que reconocer que los nacionalistas han utilizado con cierto éxito estos eufemismos

que el referéndum es un ejercicio democrático por lo tanto saludable

que votar es la encarnación de la democracia absoluta así formulado interesada y torticeramente

sin duda votar es un derecho democrático claro que lo es lo es pero no su ejercicio de cualquier manera ni sobre cualquier asunto votar es democrático claro que lo es la democracia obviamente no se entiende sin las urnas pero no bastan las urnas para que un acto sea democrático

qué es lo que falta falta el respeto a la ley porque la esencia de la democracia es el respeto a la ley es el propósito de no reconocer otra autoridad no reconocer otra autoridad por encima de los ciudadanos que la de la ley eso es la democracia

por eso se dice con razón que la democracia es el imperio de la ley otro eufemismo otra trampa del lenguaje que han conseguido

cómo me duele tener que reconocerlo pero que hay que reconocerlo que han conseguido ustedes hábilmente colar con un absoluta incuestionable es el del derecho a decidir

nadie discute el verdadero derecho a decidir a ver si nos aclaramos

todos los españoles y nosotros como vascos por lo tanto también todos los españoles lo ejercemos habitualmente

en cuarenta y uno ocasiones cuarenta y uno ocasiones los catalanes y las catalanas han acudido a las urnas para decidir sobre su futuro en cuarenta y uno ocasiones desde la democracia

quién gobierna su autonomía pero no tienen derecho a decidir qué hacemos con el conjunto de españa unilateralmente cada catalán como cada gallego o como cada andaluz o como cada vasco es copropietario de españa claro que sí que es un bien indivisión pero ningún español es propietario de la

que ocupa como ningún vecino es propietario de las calles por las que transita la autonomía otorga la responsabilidad de gobernar siempre con arreglo a la ley

porque no les dicen a los ciudadanos sobre qué tienen que decidir

ustedes qué quieren qué quieren decidir ser independientes o no mójense de una santa vez y dígannos

con argumentos con datos no hurtando el debate a los ciudadanos y aprovechándose de los eufemismos para evitar también y para hurtar un debate político y entre la ciudadanía pero la realidad por encima de todo esto hablando claro es que a ustedes este debate constitucional este debate de las leyes les importa bastante poco seamos claros me da igual que si el ordenamiento constitucional

todo esto les importa muy poco a ustedes les importa muy poco y a estos señores les importa también muy poco no les interesa

ideas y generan interesadas confusiones pues bien para terminar nosotros apelamos

al espíritu de la transición nosotros apelamos al espíritu del entendimiento ya sé que a ustedes el entendimiento y el acuerdo

prefieren el rodillo y prefieren la imposición pero nosotros apelamos al espíritu del entendimiento

entre diferentes apelamos a algo tan básico como en democracia es intentar llegar a acuerdos y no imponer trágalas

ya lo sé y lo lamento profundamente y uno de nuestros males es ese

la aceptación de la pluralidad de la sociedad vasca les produce risa la obligación y la necesidad que tenemos de buscar el entendimiento para poder convivir todos

ya lo sé ya lo sé que ustedes están en el cálculo de mayorías en el cálculo de escaños que sumen

para imponer al que suma uno menos ya lo sé pero construir una sociedad plural en base a eso es un profundo error

y al empobrecimiento y desde luego hoy cataluña hoy cataluña no es mejor que hace diez años la cataluña del año dos mil catorce no es mejor que la cataluña del año mil novecientos noventa y dos por ejemplo en la que el entendimiento

y exclusivamente responsabilidad de quienes han gobernado en cataluña todos estos años

de su gobierno y de los partidos que han apoyado esta esquizofrenia en la que han metido al pueblo de cataluña que hoy tiene más tensión en el seno de su sociedad

señor urizar puede estar muy tranquilo porque estoy muy cómoda en este debate y en cualquier otro que se desarrolle en esta cámara escuchándoles

con un profesor de sociología de la universidad de deusto recientemente que había estado de profesor visitante

en referéndums consultas y todos estos temas y me decía que al final el preguntar el hacer referéndums el hacer consultas en una sociedad democrática con un sistema representativo de partidos políticos

electoral lo dejo para su reflexión el argumento de no hay nada más democrático que votar la verdad es que

parece difícil oponerse a esta ecuación en principio votar igual a democracia es una ecuación que se ha oído en esta cámara y en esta cámara la he oído yo también en el pasado

no reside en esa premisa básica de preguntar no es tan sencillo lo he dicho en mi primera intervención

afecta a una decisión colectiva es imprescindible que las reglas sean claras y neutrales no pueden ser parciales

hay que tener claro qué y para qué se vota y para qué se pregunta cómo y quién pregunta y en qué condiciones se vota todas esas cuestiones hay que tenerlas

y yo no creo que la democracia sea mejor o más auténtica por consultar cuestiones genéricas yo creo que la democracia y la política

acuerdos concretos para obtener resultados concluyentes porque para hacer consultas no vinculantes me parece muy poco serio

la política tiene el deber de buscar los acuerdos los acuerdos entre diferentes y esos

en españa tenemos la experiencia histórica de que votar no siempre ha sido sinónimo de democracia y sino que se lo pregunten a los padres de muchos de nosotros

y no estábamos en un régimen democrático ilegalidad

son las leyes la democracia son las leyes que nos damos para organizar la convivencia igual que el derecho penal es el mínimo ético que una sociedad debe tener para garantizar la convivencia y la seguridad son los mínimos desde el paleolítico parece que algunos no se han enterado ilegitimidad porque no tienen capacidad para ello

a mí tú puedes decidir aquellas cosas para las que tienes capacidad el parlament de cataluña para hacer esa declaración de soberanía no tiene capacidad

a que si tienen tiempo lean algún manual de derecho constitucional o visiten las aulas de cualquier facultad de derecho que tengan a mano en primer curso eh no hace falta que vayan a cursos más avanzados

y se puede ser independentista las dos cosas demócrata e independentista pero no creo que se pueda ser demócrata y defender el derecho a decidir

repasen lo que he dicho porque es una argucia conceptual concebida para que una minoría se imponga a la mayoría por lo tanto no es compatible no es compatible las cosas no son tan sencillas

no valen los socialistas lo que queremos decía usted hablaba de los socialistas catalanes no hemos venido no hemos sido nosotros los que hemos traído eldebate de cataluña a esta cámara y no creo que tengamos que hablar aquí del partido socialista sino de su posición que es la que está a debate nosotros lo que defendemos es el diálogo

diálogo negociación y acuerdo lo que le decía antes

diálogo negociación y acuerdo de nada sirve plantear imposibles que fracturan la sociedad y rompen la convivencia nosotros los socialistas apostamos

que los partidos nacionalistas busquen y apuesten por la convivencia nosotros apostamos por la convivencia por el blindaje de las competencias la profundización en el autogobierno

que ahora mismo están laminados por una mayoría absoluta del partido popular y también para mejorar el pacto territorial en españa eso es lo que proponemos un acuerdo

gracias presidenta creo que esta enmienda de transacción que ustedes han firmado

claramente y resume la incapacidad absoluta del nacionalismo para resolver los problemas reales de los ciudadanos y esto vale para euskadi y vale para cataluña en lugar de dedicarse a resolver los problemas que tiene

plantean debates absolutamente absurdos y antiguos en la europa y en el mundo globalizado de hoy donde queremos vivir al menos nosotros todos juntos

y cuáles son los problemas fundamentales que tienen los ciudadanos catalanes el desempleo la precariedad los desahucios el incremento de la desigualdad el incremento de la pobreza estos son los problemas reales justo los problemas que ni el gobierno

ni el gobierno de cataluña son capaces de resolver porque todos estos problemas la desigualdad

el desempleo se resuelven mucho mejor en un ámbito común donde podamos vivir todos juntos en esa europa social democrática y transparente

se empeora la situación de los ciudadanos esto es lo que queremos decir y repetir tantas veces como sea necesario al mundo nacionalista insistía el señor egibar en aquello de los catalanes quieren votar

el famoso qué hay de malo en ello es que el asunto es otro el asunto es que

quieren tomar decisiones que no les corresponden solo a ellos sino que corresponden al conjunto de los ciudadanos españoles es decir lo que los nacionalistas pretenden en última instancia es negar el derecho a decidir al resto de los ciudadanos españoles esta es la cuestión porque

y el futuro del país y el modelo territorial del país lo decidimos entre todos los ciudadanos españoles y aquí decidiremos en virtud de nuestras competencias

por el conjunto de los ciudadanos españoles por lo tanto el nacionalismo realmente lo que quiere es privar a una parte de la ciudadanía de ese derecho la ley

democracia al margen de la ley la ley y la democracia van unidos

dejamos de pagar impuestos a partir de hoy mismo puesto que el partido nacionalista vasco y eh bildu quieren saltarse la legalidad vigente dejamos de pagar impuestos decimos a los ciudadanos que pueden no pagar impuestos si consideran que esos impuestos le son injustos por ejemplo o si hay una mayoría de empresarios que

es injusto el impuesto de sociedades vigente en gipuzkoa qué pasa que también tienen el derecho de no pagar esos impuestos la democracia y la ley van unidos no hay democracia sin ley y las leyes pueden cambiarse por supuesto que sí nosotros queremos cambiar unas cuantas

del incumplimiento de la legalidad vigente cómo pueden hacerlo

nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de resolver los problemas reales de los ciudadanos y desde luego uno de los problemas fundamentales que tiene euskadi que tiene españa

sémper yo creo que no hay nada más asociado al derecho a decidir que las políticas públicas por ejemplo

evanescente no tiene que ver con el día a día con los instrumentos necesarios para poder mejorar las condiciones de tus conciudadanos para resolver los problemas

cuanta más capacidad de decisión sobre los temas que afectan a tus ciudadanos mayor es la responsabilidad evidente el previo que ustedes cuestionan de si existe

un sujeto político el pueblo vasco o no es el motor de arranque de toda esta historia

canadá ya resolvió respondiendo a las diferentes preguntas tiene derecho a la secesión quebec la respuesta es no

derecho a ser consultada la ciudadanía de quebec sí

y la respuesta que se obtenga o sea el resultado de esa consulta obliga constitucionalmente a negociar a canadá los extremos de esa consulta

una vía política y democrática tiene cataluña

ya sabemos existen distintos anclajes que pueden

nos lo han dicho comparecientes no precisamente de editorial nacionalista en esta cámara recientemente y también con anterioridad dice usted concreción

actualizar el autogobierno vasco cada cinco años vale bien cada diez pues el dos mil cuatro

mayoritaria de esta cámara la tiene usted en un libro rojo

tiene la concreción en sesenta y nueve artículos con las adicionales correspondientes establece el modelo de relación con españa no se lo han leído evidentemente habla de un sujeto político

no le digo hasta los sesenta y nueve hasta el décimotercer artículo tiene ahí una propuesta concreta que no vincula a esta cámara evidentemente y menos a los presentes porque podemos tener y tenemos de hecho capacidad de actualizar

un ejercicio concreto dígame si no está de acuerdo por qué porque no es un planteamiento de independencia el que se hace tampoco se renuncia a la independencia porque tiene su adicional como tiene

la concreción por lo tanto no me divague concreción tiene

mendiak andereak quién está a favor del derecho a decidir o

que en cataluña no todos los independentistas son nacionalistas y menos en los últimos tiempos

en cataluña que sin ser nacionalista porque son demócratas directamente se han hecho independentistas es así

y ustedes lo saben porque lo están sufriendo allí que para ser independentista no hay que ser nacionalista es evidente y el claro exponente de todo eso cataluña beraz nik uste dut hobe

gracias señora presidenta señor urizar usted estuvo en escocia verdad

a ver el proceso no me sorprende porque ese viaje poco le ha rentado a usted digo

pero a la vista está que no porque cuando usted dice oiga fíjense ustedes en escocia

no se ha cambiado ninguna ley yo se lo dije en una ocasión y se lo repito y mi vocación didáctica va a ser impasible voy a insistir con usted

no hay constitución escrita de acuerdo por lo tanto ni por origen político ni por origen histórico ni por las circunstancias actuales legales

pero la inmensa diferencia con respecto a lo que sucede en cataluña y a lo que ustedes plantean en euskadi

además de las históricas que no son menores es el acuerdo

el respeto a la ley eso ni en cataluña lo han hecho ni ustedes lo plantean aquí dos inmensas diferencias formuladas muy brevemente tan breves que hasta estoy seguro que va a ser usted capaz

y mire señor egibar por fin se lo agradezco usted

la posibilidad que tiene usted de ser claro y hoy hemos avanzado un poco más hoy hemos visto que la concreción política del partido nacionalista vasco se remonta al año dos mil cuatro en un libro rojo se denominó plan ibarretxe

que nos llevó

de tensión política en euskadi que yo no la quiero para mi país ya sé que a usted probablemente no le importe pero yo no la quiero para mi país y lamento profundamente

que hoy en el año dos mil catorce defiende el partido nacionalista vasco mire

el país vasco nuestra comunidad autónoma cómo no va a ser un sujeto político claro que lo es

san sebastián irún ormaiztegi no son sujetos políticos claro que lo son

álava no se puede independizar de euskadi por mucho que una mayoría de alaveses quisieran o no pero no puede suceder eso

no lo permite euskadi nuestra comunidad autónoma no se puede independizar de españa no porque no haya una mayoría de vascos que no lo quieran o sí sino porque la ley no lo permite y para que álava se independizara de euskadi y para que euskadi se independizara de españa habría que cambiar la ley

y habría que acordar cosas habría que debatir habría que reflexionar

y ustedes cuando le digo que hurtan el debate se lo digo porque esa formulación tan genérica y políticamente burda del derecho a decidir

fundamental cuándo hablan de independencia eso qué significa qué significa en términos sociales

qué significa en términos de relaciones internacionales qué papel pasa a jugar euskadi en el contexto internacional en una hipotética independencia sobre eso ustedes no hablan

ese escenario sería mejor que la convivencia que el acuerdo y el entendimiento no nos dicen por qué una situación como la que estamos viviendo en cataluña de tensionamiento político extremo al que la han llevado los políticos insisto catalanes los nacionalistas catalanes

la peor situación social y político en su historia democrática reciente

la tremenda paradoja es que hoy la convivencia en cataluña es infinitamente peor que en el año mil novecientos noventa y dos y le pongo esa fecha porque me parece una fecha especialmente significativa en la que existía una convivencia normal y natural de símbolos de identidades de sentimientos de pertenencia hoy eso se ha quebrado lo han quebrado los nacionalistas y lo han quebrado a base de meter el dedo en el ojo a base de apelaciones genéricas a no se sabe quién

es terrorífico y tremendo cómo la apelación permanente a la identidad y a las tripas no solo provoca

sino que empeora la calidad de vida de los ciudadanos y eso es malo para cataluña

y el modelo del partido popular no es el del plan ibarretxe y lamento que el del partido nacionalista vasco lo sea nosotros les hemos ofrecido acuerdo les hemos ofrecido

reformar nuestro estatuto si es necesario para mejorar la herramienta de autogobierno para mejorar la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos y ustedes nos vienen con el plan

gracias presidenta con posterioridad a la presentación de esta iniciativa han surgido informaciones que hablaban

del régimen electoral general digo que se hablaba porque no se ha confirmado ni se ha desmentido son informaciones periodísticas que se dejaba a un lado la norma que preveía la elección directa de alcaldes y alcaldesas que alteraba

las mayorías electorales en los ayuntamientos isiltasuna mesedez como decía esto son informaciones que no han sido oficialmente

y no sabemos tampoco si esa decisión caso de haberse adoptado es consecuencia de la oposición frontal del partido socialista y del resto de la oposición justamente escandalizada por el pucherazo legislativo

de cara a las próximas elecciones municipales en cualquier caso lo que sí parece claro es que esta cuestión

ha quedado al menos retirada de la circulación de la opinión pública inmediata y eso que es muy positivo esperemos que sea para siempre y por qué pues porque las normas y los procedimientos democráticos están para algo también aquí señor sémper y no pueden forzarse

también aquí y el gobierno del pp ha tratado de retorcer las normas y procedimientos del sistema de libertades que en una democracia son tan importantes

y ese es el pecado original de los cambios que este gobierno quería o quiere introducir en la ley electoral su déficit democrático la cuestión que está en juego no es la de saber si los cambios que se pretenden se proponen y benefician más a unos u a otros aunque parece que no hace falta ser un lince para sospechar

o lo estaban para que el pp se perpetúe en el poder tampoco lo es saber si los contenidos que se proponen pueden ser defendibles y debatidos en un marco de respeto a las reglas del juego democrático pero es que el problema precisamente es que en esta cuestión

y hay cosas que no se pueden hacer con mayoría absoluta o sin mayoría absoluta es la primera vez la primera desde que vivimos en democracia

algo troncal en un sistema democrático de manera unilateral y sin consenso político y también la primera vez que un gobierno pretende cambiar a toda prisa una ley electoral para condicionar las próximas alcaldías de los ayuntamientos en vísperas a poco más de seis meses de unas elecciones locales

unos minutos antes de terminar el partido cuando además no existía demanda política para ello ni razón alguna que aconsejara los cambios

en cálculos partidistas y también es la primera vez que un gobierno trata de alterar de manera unilateral

y un tema tan troncal en nuestra democracia como las relaciones entre mayorías y minorías que son las que han regido hasta el presente y por cierto con muy buen criterio democrático quizás por eso la oposición política se encuentra por primera vez en la obligación de recordar que las mayorías electorales

en manos de quien obtiene un cuarenta por ciento de los votos sino más bien en el sesenta por ciento restante que por cierto tiene todo el derecho a trabajar para convertirse

por eso sorprende que este gobierno y su partido nos digan que lo que pretenden es más democrático que quieren que los alcaldes se elijan por los ciudadanos y no en los despachos

como si esto fuera una especie de reclamación y clamor ciudadano y no hubiera salido esto sí precisamente de unos despachos

y a medida además de sus propias conveniencias electorales y lo que nos llega al alma y nos ofende especialmente es que el partido popular y su gobierno hagan de los señores de bildu la prueba del algodón de la limpieza democrática de sus planes de este modo hemos visto con sorpresa y con desagrado he de decirle

como antes arancha quiroga nos digan que el hecho de que el nuevo sistema de elección de alcaldes pudiera favorecer a bildu es una prueba de que no obedece a ningún cálculo electoral

con tal de mantener a sus alcaldes en los ayuntamientos que ahora gobiernan en el resto de españa y eso es una prueba de hasta dónde llegan los principios de quienes se han venido erigiendo en campeones de la lucha contra el terrorismo

de cómo se lucha contra el terrorismo y cómo otros traicionan o traicionábamos a la lucha contra eta

que está guiada solo por intereses exclusivamente partidistas al margen del consenso político y en agresión directa a la autonomía de los ayuntamientos y a la democracia municipal y supone una vuelta de tuerca más en la agresión constante del gobierno de rajoy a la autonomía local algo que afecta y mucho a los ayuntamientos vascos y también a nuestras competencias autonómicas en el ámbito municipal

ha sido especialmente persistente ha sido en el intento continuado de dejar sin voz y sin capacidad política real a los ayuntamientos sacó adelante

la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que no tenía otro fin que desmantelar los servicios públicos que los municipios

después anunció una ley de demarcación y planta judicial también con el objeto de desvitalizar la actividad judicial de los ayuntamientos que han sido cabeza de partido judicial

a unos meses de las elecciones municipales nos anuncia espero que se confirme el anuncio de la retirada y hasta ahora lo que sabemos es que nos anuncia que pretende modificar la loreg

en definitiva este gobierno nos esta acostumbrando a una forma de hacer política en la que la transparencia y la defensa de los intereses generales brilla por su ausencia y pensamos que hay que manifestar aquí en esta cámara en el parlamento vasco un no rotundo ante esta forma de actuar ante esta forma de hacer política

de sus normas y de sus reglas de juego y pensamos que hay que decir un basta ya a quienes tratan de utilizar la mayoría absoluta de que disfrutan para degradar la calidad de la democracia a mí me gustaría mucho que usted saliera después aquí a esta tribuna

que esta ley ha quedado definitivamente aparcada por el gobierno de españa créame que me gustaría muchísimo

presentar esta iniciativa pero en todo caso tenemos informaciones periodísticas tan potentes en un sentido como en el otro no desmentidas oficialmente por ninguna voz autorizada dentro ni del gobierno ni del partido popular y aquí hemos presentado una iniciativa que hemos intentado pactar de forma

esta enmienda de transacción que presentamos conjuntamente y que afortunadamente saldrá adelante en este parlamento eskerrik asko

sí gracias presidenta efectivamente no parece que el gobierno de españa haya abandonado definitivamente la propuesta que hoy debatimos no tenemos conciencia de este hecho al menos aunque es posible dada la situación en la que estamos

teniendo en cuenta su soledad y las criticas recibidas es posible que finalmente la aparte pero en todo caso creo que mientras siga esta propuesta amenazante pues yo creo que es buen momento para debatir sobre la cuestión

las leyes pueden cambiarse las leyes electorales también pueden cambiarse es más las leyes electorales deben cambiarse y nosotros mismo lo hemos propuesto

en andalucía a través de una ilp en asturias y aquí mismo hemos propuesto modificaciones de distintas leyes electorales

electorales algo en lo que creo que acertadamente incide la justificación de la iniciativa del grupo socialista y es que debe hacerse con el máximo consenso

y siempre que se plantee cualquier tipo de modificación legal y en concreto una modificación de las leyes electorales entiendo que debe impulsarse para

e igualdad de voto para que la transformación de votos en escaños

o para impedir algo que sucede en la actualidad en el congreso de los diputados y es que hay partidos políticos con menos votos que otros que sin embargo

las leyes electorales o para introducir el desbloqueo de las listas

para mejorarlas y las leyes electorales también para hacerlas más democráticas más proporcionales para que la transformación de votos en escaños sea más razonable más proporcional para esto por lo tanto hay que cambiarse las leyes y ya digo que nosotros en concreto hemos

legales y la modificación también de la loreg en relación a las elecciones al congreso de los diputados algo que por cierto han venido defendiendo en los últimos meses

y el tribunal constitucional la necesidad de reformar la ley electoral general por lo tanto los partidos políticos no se ponen a ello nosotros hace aproximadamente dos o tres días lo defendimos y la mayoría de los partidos políticos en concreto el partido popular

si no se hace caso a upyd por qué no se hace caso al consejo de estado al consejo de europa

de la ley electoral general o en relación a la propuesta que hoy

la elección directa de los alcaldes está en nuestro programa electoral pero desde luego no del modo en que lo propone el partido popular de un modo claramente a como ha venido a plantear el partido popular esta cuestión nosotros lo que proponemos es una votación a doble vuelta

se hace una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados esto yo creo que es una propuesta razonable que mejoraría el sistema y que además no debería quedar ahí sino que habría que acompañarla con otra serie de modificaciones como por ejemplo limitar a dos el número de mandatos

que alcaldes diputados autonómicos o diputados nacionales o reducir competencias del alcalde para que tenga menos poder y por lo tanto se produzcan menos abusos o reformas para que la administración municipal sea más profesional esto es lo que dice nuestra propuesta

y hemos registrado una enmienda de totalidad que trataba de explicar qué era lo que nosotros proponíamos pero yo entiendo que en el debate de hoy no es lo importante

upyd sino sobre todo decir que para cualquier tipo de reforma que se proponga hace falta el máximo consenso y respetar los tiempos

una reforma de la ley electoral en estos términos y además

a apenas seis meses de que se produzcan esas elecciones

dijimos condicionada a que se ponga en marcha a partir de las próximas elecciones generales esto es yo creo que lo importante que se debate hoy aquí y lo que

compartimos consenso y respeto a los tiempos hace una semana llegamos a un texto común en el congreso de los diputados upyd planteó una moción y finalmente se llegó a un texto común que fue firmado

y que fue firmado también por el partido socialista y que fue votada por todos los grupos del congreso de diputados salvo el partido popular

hoy aquí una propuesta de mínimos

máximo consenso y respeto a los tiempos no se puede plantear una reforma electoral a apenas seis meses de las próximas

y voy terminando a la justificación de la iniciativa planteada por el grupo socialista no compartimos todo lo que se propone ahí pero lo fundamental como he explicado en concreto compartimos lo que se dice ahí en relación a que tan solo nueve meses de las próximas elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por parte del gobierno

y prepotente o cuando se dice que únicamente responde a las urgencias del partido del gobierno para perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas

sobre la elección de los alcaldes modificando urgentemente la loreg

meses de las elecciones locales todo esto lo compartimos otra serie de cuestiones no pero esto sí y creo que es lo fundamental de lo que hoy se vota

la propuesta del partido popular hace algunas semanas como un fraude antidemocrático y un pucherazo electoral y que no tenía otro objetivo que blindar

protegerse de partidos políticos emergentes o de su propio descenso electoral y creo que así lo entendimos todos los partidos políticos que ese era el objetivo fundamental del partido popular desde luego no regenerar la democracia como trató de vendernos el partido popular sino blindar sus

la irrupción de partidos más pequeños o partidos nuevos y por lo tanto mantenerse en el poder a través de un pucherazo electoral y de un fraude antidemocrático en fin yo

una recomendación al partido popular que por cierto puede ser una recomendación para todos los partidos políticos si quiere mantenerse en el poder creo que lo que debe tratar de hacer o lo que debemos tratar de hacer es tratar de convencer

de que nuestras propuestas son mejores que las de los demás partidos políticos en definitiva argumentar y ganarse el voto de los ciudadanos en lugar de impulsar

pucherazos electorales esto es lo que debería hacer el partido popular si efectivamente quiere mantener sus ámbitos de poder mantener sus alcaldías o

argumentar para recibir más votos es más cansado pero es más democrático eskerrik asko maneiro jauna

alkatesen hautaketari dagokiona porque como señalaban algunas de las personas que me han precedido

y la reflexión más amplia no ya desde nuestro punto de vista sino desde el punto de vista del fondo monetario internacional y así lo dijo en el dos mil trece

que el problema para reformas estructurales que se tienen que llevar a cabo en el estado español dos serios riesgos por delante el primero las revueltas ciudadanas que pudieran devenirse de la aprobación de dichas medidas estructurales el segundo la caída o la erosión

tienen ustedes que traer a cabo esta reforma y otras que le han acompañado

como podría ser la reforma de la ley de bases del régimen local o directamente por los pucherazos como pretendía ser la alteración del censo electoral en la comunidad autónoma vasca para intentar conseguir aquello que los ciudadanos les niegan sistemáticamente que es un mayor apoyo electoral y decía que esto es una alcaldada

visten como una mayor capacidad de decisión no quisiera meterme en el terreno

de los alcaldes de la figura del alcalde en una ley todavía por definir ustedes señalan que aquel que obtenga según las últimas informaciones aparecidas en prensa

respecto a la mitad más uno que defendían en su inicio pueda hacerse

y no se sabe si con una mayoría absoluta del pleno de dicho municipio en esta cámara es reiterado el uso que se hace

sin embargo ustedes a la hora de proponer esta reforma de la ley electoral desde luego no se han mirado a los países nórdicos donde impera un sistema proporcional y de listas abiertas justo todo lo contrario que el que aquí tenemos junto con portugal que es de listas cerradas y bloqueadas que no pueda darse tal cosa ustedes se han encargado durante mucho tiempo por eso decía antes que desde mil novecientos setenta y ocho de que el sistema que rige la vida municipal sea un sistema donde el que entra tiene barra libre para hacer lo que le de la gana durante cuatro años

esa es la triste realidad porque las mociones de censura solo aquí solo aquí en ningún otro lugar requieren de la presentación de candidato con mayoría absoluta eso que puede parecer una cuestión menor es una cuestión de enorme trascendencia y ustedes se encargaron muy mucho

solo se puede hacer por mayoría absoluta evidentemente ni quieren oír hablar del principio de revocación del principio que permitiría a la ciudadanía que pudiera desplazar a algún alcalde en el caso de que estuviera ejerciendo mal su función probablemente si así fuera

pero intereses de partidos probablemente manden la realidad de todo esto es que ustedes en el dos mil once consiguieron la mayor concentración de poder municipal que se ha dado en la historia del estado español

que actualmente están integrados dentro del estado español y

para desplegar todo el catálogo de reformas estructurales que ustedes tenían que llevar a cabo

lo que quizás desde aquí vemos con cierta distancia pero tiene pleno sentido las huelgas en madrid por ejemplo por las basuras o por la privatización del agua del canal

así se entiende porque desde lo municipal han empezado usted a abrir las puertas al capital privado para vaciar el poder público y probablemente esta aprobación si finalmente la hacen y yo estoy un poco perdido en este debate en una lógica porque hasta donde yo sé el partido popular y el partido socialista a través del secretario de estado para las cortes

han creado una especie de comisión para ir hablando todas las reformas que dentro de lo que llaman regeneración democrática se tienen que llevar a cabo y que esta ley no es que haya quedado fuera de ese ámbito de negociación sino que la han dejado para más adelante porque parece que el consenso es menor

la virulencia hoy del partido socialista poniéndose en frente de quien probablemente aspire a que sea su aliado digo yo después de tanto canto al diálogo al acuerdo y a la negociación poco sentido tendría la propia existencia y la asistencia

pero en cualquier caso si esta ley la aprueban sea en solitario con su mayoría absoluta o sea en colaboración con el partido socialista como en contraprestación hicieron hace unos años con el artículo ciento treinta y cinco de la constitución que todavía hoy

a estas cosas tan duras del pago de la deuda y de tener menos dinero para nuestros conciudadanos y conciudadanas

y no necesitarían del fomento de operaciones tan poco edificantes en lo democrático

pero decía que este no es el único caso la ley de régimen de bases locales también ha sido una cacicada de primer orden y no menos importante que esta no es menos importante despojar de decisión política a los municipios y traspasársela a las diputaciones provinciales todavía más grave en el caso del estado español donde las diputaciones provinciales no son ni siquiera legibles mediante sufragio sino que son

y que solo están sirviendo para que por ejemplo en el caso de la diputación de alicante nutrida durante mucho tiempo de cantidad de imputados por el caso gürtel y eso nos parece bastante grave es bastante grave que el gobierno pueda intervenir municipios de menos de veinte mil habitantes porque entienden que no están aplicando bien o que no están siguiendo

nadie más y es también bastante gráfico

el ministro montoro dijera algo así como son demasiado opacas

y no hablaba de las tarjetas negras de bankia créame que no hablaba de las mancomunidades de las mancomunidades que permiten dotar de servicios a pequeños ayuntamientos que por sí solos

van a eliminarlas y también se han planteado reducir un treinta por ciento el número de concejales es decir aumentar el número de votos necesarios para obtener el acta de concejal no es una medida que favorezca la pluralidad más bien todo lo contrario porque el problema no son los gastos elevados que pueda suponer tener un treinta por ciento de concejales más según lo plantean ustedes sobre todo cuando acabamos de ver ayer mismo

su presupuesto parece que las prioridades de este gobierno las prioridades de algunos pasan por tener más dinero para armas en lugar de tener más atención a los municipios

por ir terminando nuestra propuesta pasa también por evitar que se produzcan pucherazos electorales como el que se pretendía hacer alterando el censo electoral y que también es una de las amenazas constantes con las que el partido popular nos intenta

una amenaza que si no la lleva a efecto será porque sabe que los votos que de algún sitio quite también allí los puede necesitar viendo que la trayectoria del partido popular no es precisamente

se puede esperar nuestra propuesta es muy sencilla más funcionamiento abierto plural y democrático de las instituciones municipales al servicio de la ciudadanía y al respeto de la voluntad popular antes durante y después de las elecciones incluyendo el principio de revocación más

a las empresas que hacen de la especulación y de la obtención de recursos públicos para sus fines privados una vía de desarrollo y más abrir las puertas a los ciudadanos y ciudadanas

en diferentes entes en los que se agrupan y más derecho a que se organicen en base a las necesidades de euskal herria y por supuesto más participación ciudadana y más democracia directa

señalaba el señor pastor que a bildu se le ha querido conceder un protagonismo por parte del partido popular para explicar no sé qué decisión yo creo que se equivoca el protagonismo de euskal herria bildu y también se equivoca la señora santamaría esa sí lo hace

la señora quiroga parece que fue disculpe señor sémper el protagonismo a euskal herria bildu se lo dan los ciudadanos

porque al final esto se ha convertido no una exposición de planteamientos políticos sino en un pim pam pum contra el partido popular y además

y en otras en base a una especie de política parlamentaria preventiva

es verdaderamente complicado también debatir sobre especulaciones porque les voy a decir una cosa no hay ninguna propuesta no hay

de la loreg no existe estamos debatiendo sobre especulaciones sobre manifestaciones políticas en algunas ocasiones

sobre informaciones periodísticas pero no podemos debatir sobre

a caer sobre la democracia española no existe documento no existe propuesta lo que existía era

y en menor medida del gobierno yo no recuerdo a nadie del gobierno que se haya manifestado pero

abierta la puerta para modificar la loreg y permitir efectivamente que

fuera alcalde manifestado y formulado de esta manera tan genérica y explico por qué

habla de retorcer el sistema de libertades pecado original un déficit democrático

en dos ocasiones han modificado la loreg sin consenso y en una de ellas

en dos ocasiones lo han hecho señor pastor nosotros nunca claro

cuesta mantener un debate constructivo al menos y es lo que a mí me gustaría que hoy

ya han aprovechado para decir todo lo que tenían que decir pero vamos a intentar aportar y a mí me gustaría les hago un ofrecimiento para eso mi intención no es reformular

sí por lo menos vamos a intentar establecer y tener un debate constructivo

al parecer y yo me he interesado le animo señor pastor a que usted haga lo mismo en llamar a mis compañeros en el congreso de los diputados para saber qué es lo que pasa

ante un evidente desprestigio y cabreo generalizado por parte de los ciudadanos hacia el ejercicio de la política en la actualidad

más que evidente necesidad de reformar algunas de nuestras instituciones

es que el partido popular el grupo parlamentario popular y el grupo socialista en el congreso de los diputados invitando al resto de formaciones políticas van a debatir sobre un paquete de medidas de regeneración democrática

virtud de la cual el partido popular quería reformar la loreg para permitir que los alcaldes

y eso al parecer despertó la conocida reacción contraría ni tan siquiera a sentarse a debatir por parte del partido socialista se ha dejado de lado

necesarias de transformación de regeneración democrática es así de regeneración democrática que yo y nosotros creemos que le hace falta a nuestro sistema esta reforma de la loreg

claro que no y el que lo haya planteado así en mi opinión se equivoca

después de más de tres décadas de vigencia de esta ley nosotros defendemos y nosotros creemos que el sistema merece de una pensada dicho de una manera vulgar merece que nos sentemos para ver si somos capaces de aplicar las medidas necesarias las reformas necesarias para que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas en este caso concreto nada más y nada menos

manera más fidedigna posible en cuanto a quién es el alcalde como sucede en francia como sucede en alemania como sucede en italia como sucede en el reino unido es decir como suceden en lugares donde no están demasiados locos o desde luego no están

y tienen un sistema diferente y la propuesta es abierta yo soy partidario de que hablemos de listas abiertas que hablemos de segunda vuelta

el debate está abierto por qué tenemos miedo al debate dónde está el problema a debatir señor pastor

de una reforma insisto en unas elecciones tan singulares como son las municipales en las que probablemente los ciudadanos a la hora de votar a un candidato les influye mucho más

o incluso la ideología que manifieste ese candidato tener le importa mucho más

por qué no le damos una vuelta para desbloquear algo que ahora esta bloqueado o que en cualquier caso ha servido hasta ahora pero que merece y necesita una reforma

que no es regenerar la democracia claro que no señor matute pero sí es mejorar el sistema de elección de algo tan singular como es el alcalde pues bien este planteamiento

es el planteamiento que lleva al partido socialista a calificar como retorcer el sistema de libertades pecado original déficit democrático eso es profundamente injusto señor pastor porque yo entiendo que esta

y que ha querido traerla sí o sí que había que traerla aunque ya

y entiendo que había que traerla y entiendo que ni el desmentido oficial

ese sí por los portavoces parlamentarios en virtud del cual no se iba a debatir sobre esta reforma pues le ha servido a usted para retirar este debate pero bueno debatamos cuál es problema para mejorar

cuál es el problema para que nos sentemos todos e intentemos reformar la elección de una figura insisto tan singular y tan personalizable si me permite la expresión como es quién va a ser el alcalde de un pueblo

es que hay miedo a que los partidos políticos pierdan poder porque yo quiero que pierdan poder

quiero que influya más el candidato nosotros queremos que tenga más importancia

quien se presenta antes que por el partido por el que se presenta

que son las elecciones municipales por qué no hablamos efectivamente de segunda vuelta por qué no pero por qué no hablamos de listas abiertas por qué un portazo señor pastor al debate

por qué ese sarpullido que les entró a ustedes y que hoy han reflejado todos

a debatir sobre algo que lo que quiere es modernizar el sistema de elección de nuestros alcaldes de verdad que no lo entiendo y

terminar mi intervención refiriéndome al señor matute hablando de

hablando de la evolución electoral de unos y otros usted es experto usted es conocedor de lo que es estar en una formación que va en franco descenso hasta la desaparición y luego cambiar

a mí me gustaría saber del decálogo que usted ha manifestado aquí del decálogo que usted ha expresado aquí con respecto a lo que quiere hacer bildu o a lo que haría bildu en los ayuntamientos

de ese decálogo qué están ustedes cumpliendo por ejemplo en san sebastián muchas gracias

gracias presidenta yo quiero reseñar el esfuerzo que ha hecho el señor sémper en esta tribuna porque la verdad es que ha hecho un papelón ha hecho un papelón porque esto no es ninguna clase

con motivo de la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local cuando nosotros ante las noticias aparecidas trajimos el debate aquí nos dijeron lo mismo

se aprobó en los términos nefastos que nosotros denunciábamos que se iba a aprobar exactamente igual y esto no es algo que nos hayamos inventado los socialistas

en la que ha habido declaraciones muy contundentes del propio presidente de gobierno

para el dos mil quince sí señor sémper sí reproducción literal

ya sé que ha veces son plasmas intoxicaciones informaciones varias noticias de agencia declaraciones de todo tipo plazos que se barajaban todo eso conforma un estado de opinión que ustedes han querido crear y que tenían intención real de poner en marcha si les salía y desde luego no me quiera decir usted que esto era simplemente una reflexión sobre la mejora de la administración local

mira donde se refleja en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento la fuerza electoral del pp y dice todavía nos da para ser primer partido aunque no tengamos mayoría absoluta vamos a cambiar la ley

y conservamos una gran parte del poder municipal a eso responde a cálculo electoral puro y duro

las bondades ni los costes ni los beneficios de las modificaciones que plantean

e intentar cambiar una cosa tan importante como una ley electoral a pocos meses vista de unas elecciones municipales porque si fuera por coste beneficio con la aplicación de la medida que ustedes proponen probablemente estos señores y estos no nos hubieran robado ni la alcaldía de lasarte ni la de trápaga

pero no se trata de esa discusión se trata una discusión como le decía de principios democráticos de hablar con tiempo con racionalidad

electorales sobre todo porque son temas muy importantes

y yo me alegro mucho de que usted me diga que esto es simplemente un anuncio que era un globo sonda que era explorar

señor sémper ningún miedo al debate todo lo contrario lo que queremos es que se haga de forma limpia y como corresponde no en vísperas de una campaña electoral

autonómicos o locales en este caso porque entonces está absolutamente contaminada yo no conozco por cierto esas modificaciones de las que usted me habla de electoral pero en todo caso si ha habido alguna

que se habrá pactado con algún grupo político más que el partido socialista con toda seguridad con toda seguridad

radicalmente distinta y aquí hay que hablar simplemente de esto de sentido común

quiero creerle a usted cuando me dice que esto se ha quedado aparcado porque también les hemos oído ustedes aquí hacer defensas firmes del concierto económico que luego su partido en madrid

y se la salta a la torera o iniciativas legislativas de este parlamento como la referente al desempleo de los parlamentarios que también ustedes comprometen aquí su posición no se respeta por parte de su partido en madrid espero que esta vez eso no sea así y que sea cierto que estas y otras negociaciones que mejoran la democracia
se puedan hacer cuando corresponde y no con cálculo electoral eskerrik asko pastor jauna

entre grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos porque compartimos lo fundamental de lo que al menos pensamos nosotros se quiere decir en esa transaccional por lo tanto votamos a favor

nos parece mala porque no hay consenso suficiente para llevar a cabo una reforma de estas características porque se plantea cuando faltan apenas nueve meses

elecciones municipales y porque en definitiva no es el momento adecuado ni en el fondo ni en la forma por eso vamos a votar a favor de la transaccional

suponga una invasión competencial de la propuesta planteada por el partido popular no pensamos que exista en fin invasión competencial en todo caso ya digo que

eskerrik asko presidente andrea yo tengo que agradecer al señor sémper porque en dos frases a sintetizado

esas clases de tutoría personalizada que va ofreciendo por ahí ha señalado

ante el enfado de los ciudadanos es necesaria la reforma de las instituciones que no son paquetes de regeneración o con paquetes de regeneración democrática esa es una de las ideas que ha señalado

cuando permiten que las instituciones públicas funcionen solo en la dirección de servicio a los intereses privado y especulativos la gente se cabrea y como la gente se cabrea ustedes temen perder

temen que ustedes pierdan el control de las instituciones porque como le señalaba en el dos mil once

de poder político municipal y les ha permitido aplicar el calendario de reformas el calendario de recortes

de la manera en que quería el poder económico y por eso se han ido privatizando servicios públicos esenciales y se ha ido privatizando el servicio de recogida de basuras y se ha ido privatizando también el abastecimiento de agua y esa en su agenda política eso es lo que hay debajo de esto no el debate falso sobre si las voluntades las no voluntades el diálogo acordar lo que gente quiere lo que la gente quiere y le dice a usted seguramente que es muy diferente

muy diferente probablemente usted cuando ve el escándalo de las tarjetas se escandaliza y es eso es en lo único que estamos de acuerdo

comprar comido en un supermercado ha sido condenada a quince días y a usted probablemente pues le parezca que si no se hubieran excedido tanto los señores de bankia la cosa no habría salpicado tanto a algunas personas más cercanas a su partido esa es la manera diferente de entender la sociedad pero hay otra cuestión usted hablaba

evidentemente con esta medida y otras parecidas como las que he señalado ustedes

perfeccionarlo hacerlo más ajustable a sus necesidades no a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas por eso ustedes no se atreven a hablar de democracia directa para qué

de qué iban a sostener a la señora ana mato por ejemplo estos días después de la que ha liado con lo del ébola

qué gobierno iba a ser capaz de sostenerla en el ejercicio del poder como están haciendo ustedes por eso temen la apertura a la democracia y porque además saben que desde que ustedes tienen ese poder municipal la defensa de lo público es una cuestión que apenas aparece en la agenda de la actuación política en esas instituciones porque están más preocupados en que las grandes entidades antes constructoras ahora ligadas a servicio

a los ciudadanos y a las ciudadanas y esa es la realidad y por eso plantean esas reformas y por eso yo no me he limitado solo a hablar de esta reforma no nata

porque buscan más consenso yo les pediría que ya que tiene mayoría absoluta la ejerzan y la ejerzan para todo eso que he dicho para favorecer la democracia directa para favorecer el principio de revocación

no ha pensado en el servicio que por ejemplo aquí en euskal herria pueden prestar las mancomunidades y con las que incluso creo que usted no estará en desacuerdo pero que sin embargo tiene que aceptar como incómoda por la realidad de foto que le plantean y me hablaba de decálogos que pudiéramos trasladar sobre instituciones en las que gobernamos le he hablado antes del apoyo municipal le podría decir ahora

por la duración de los mismos que haya un proceso participativo en el que han participado más de cincuenta y cuatro reuniones

o que haya habido referéndums la palabra maldita parece para el partido popular para testar

que a los ciudadanos donostiarras pero más allá de eso únicamente señalar el sentido del voto

el partido del gobierno que el partido popular lanzara globos sonda como usted ha dicho que si a explorar no no política manifestada por el partido que hay que reformar el sistema para que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas en unas elecciones municipales por ejemplo en los pueblos sea mejor reflejada

creemos que se puede reformar para mejorar este objetivo político que ha expresado el partido popular y en ese espacio cabe mucho debate y lo hemos hablado desde listas abiertas

es decir doble vuelta hay un debate por explorar que ustedes

y yo creo nosotros creemos que es un error creemos que es un error es verdad que el partido popular

tiene dos condicionantes para gobernar y para tener las alcaldías primero que la gente les vote eso es algo que nos afecta a todos

es verdad para nosotros para el partido popular el listón de gobierno está en la mayoría absoluta no nos vale con sacar un cuarenta por ciento o un cuarenta y cinco por ciento a nosotros se nos exige mayoría absoluta es verdad

todos los diferentes aunque no tengan nada que compartir y son capaces de poner al que ha salido en tercer o cuarto lugar de alcalde con tal de que no gobierne el partido popular

pesado que es el que lleva el partido popular en el resto de españa eso es cierto pero bueno

es mucho más democrático por supuesto que gobierne el tercero o el cuarto como alcalde con tal de que no gobierne

seguro que verdaderamente democrático señor pastor

que siempre es buen momento para debatir y para acordar si lo que se acuerda es bueno

si lo que se acuerda mejora el sistema en este caso de elección de un alcalde

porque además la experiencia nos dice que cuánto tardamos en llegar a acuerdos

las ponencias y nada más y nada menos imagínense lo que van a tardar o lo que vamos a tardar para reformar la loreg en este aspecto o en cualquier otro cuando se pongan a ello lo que va a costar cuánto tiempo cuántos meses llevamos hablando de reformas de regeneración democrática

y algunas a las que se ha llegado a acuerdo y cuánto nos va a costar al resto anda que si fuéramos rápidos si fuéramos rápidos

el escenario cambiaria pero yo creo y nosotros defendemos que se puede abrir ese debate

porque no es y a hora las disculpas se las paso al señor matute por haberme explicado mal no es que ante

que también que todos reaccionamos muchas veces también cuando vemos cómo caen algunas cosas ante la ciudadanía

que también lo que creo es que el sistema tal y como está planteado ha funcionado correctamente hasta ahora y ahora necesita un nuevo impulso soy de los que lo cree una modernización una mejora porque los tiempos han cambiado

porque lo que antes los ciudadanos aceptaban como normal hoy ya no lo aceptan como normal y eso es bueno que desde la política se reaccione y se responda positivamente

qué hay de malo en responder ante una exigencia ciudadana dónde está el problema cuando se detecta que la ciudadanía está cabreada o que no comparte una

de funcionar de determinadas instituciones dónde está lo malo que se reforme y que se transforme cuál es el problema al contrario hay que reaccionar y hay que responder y en este caso concreto es lo que yo le decía mire yo de verdad yo creo que cuando o quiero creer a lo mejor soy un iluso yo creo que sobre todo en los municipios más pequeños pero también en las ciudades grandes

por encima de la sigla por encima de lo que decía antes de la ideología que diga defender

está la confianza que le inspira el candidato en sí y muchas veces

porque ese candidato el candidato a su ayuntamiento le convence más incluso por encima

démosle una vuelta démosle una vuelta para que eso también se garantice

insisto en un ayuntamiento o en un municipio está mejor reflejada ese es el debate

del partido popular créanme que está solo en su cabeza muchas gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta volvemos a traer un asunto que fue debatido

hace no demasiado en concreto el día veintinueve de mayo y alguno se preguntará por qué volvemos a traer el mismo asunto cuando apenas han pasado tres meses o cuatro

se ha cerrado en falso y han pasado algunas cosas desde que se debatió aquella cuestión efectivamente el pasado día veintinueve de mayo el pleno de este parlamento aprobó la enmienda de totalidad de upyd a una iniciativa original relativa a los incentivos fiscales denominados vacaciones fiscales qué es lo que se aprobó en aquel pleno se aprobó que este parlamento

la multa de treinta millónes e euros impuesta por el tribunal de justicia de la unión europea

trece de mayo de dos mil catorce y censuramos el parlamento censuró la puesta en marcha de las denominadas vacaciones fiscales declaradas ilegales por la unión europea

injustificable e irresponsable en la recuperación de las ayudas empresariales por parte de las diputaciones forales motivo este ultimo por el cual el tribunal de justicia de la unión

la multa efectivamente esto podría haber quedado así pero por qué insistimos en traer este asunto a debate porque efectivamente el día veintitrés de dos mil catorce el gobierno vasco y las diputaciones forales pactaron en el consejo vasco de finanzas el reparto en el pago de la multa impuesta por el tribunal de justicia

el más mínimo atisbo de autocrítica por parte de las instituciones representadas en dicho órgano no ha habido el mínimo atisbo

especialmente de quienes fueron los responsables de que en última instancia los ciudadanos vascos tengamos que pagar treinta millónes de euros es decir seguimos sin escuchar a ningún representante político responsable sin explicar a los ciudadanos quiénes son efectivamente

deban detraer de sus necesidades treinta millónes de euros nadie ha pedido perdón por la tardanza injustificable en la recuperación de las ayudas

impuesta nadie ha explicado nada a los ciudadanos nadie ha asumido su responsabilidad política nadie ha admitido que se haya equivocado

la multa se impone como consecuencia de que en un momento determinado los responsables políticos que dirigían las distintas diputaciones forales deciden no cumplir la sentencia y no recuperar las ayudas empresariales concedidas en una actitud que nosotros consideramos absolutamente y consecuencia de esa actitud absolutamente irresponsable los ciudadanos tenemos que pagar treinta millónes de euros con lo cual pensamos que esto no puede quedar así han pasado semanas han pasado meses y no queremos que los responsables de esta situación se vayan de rositas por esto hemos vuelto a traer esta iniciativa a este pleno para que este parlamento se reafirme en lo que

alguna cosa más en concreto para que este parlamento inste a los representantes de las diputaciones forales responsables de la multa impuesta

de dos mil catorce a que asuman públicamente su responsabilidad política y admitan que actuaron de modo injustificable al negarse reiteradamente los sucesivos requerimientos del tribunal y planteábamos también que este parlamento inste a la fiscalía del tribunal superior de justicia del país vasco a investigar

superado porque la fiscalía ya lo está investigando cosa que nos parece correcta hay quien considera que este parlamento no tiene que instar a la fiscalía a nada

considerada una decisión política de este parlamento instar

a investigar determinada cuestión en todo caso ya digo que ya lo está haciendo y en todo caso considero que lo importante es volver a decir que

asumir sus responsabilidades políticas los responsables de esta multa de treinta millónes de euros por lo tanto y para terminar hemos sido víctimas de unos políticos fundamentalmente el partido nacionalista vasco profundamente

irresponsables tramposos e incluso mentirosos que trataron de engañar a la unión europea y como consecuencia de ello tenemos que pagar treinta

responsabilidades políticas esto no puede quedar así más allá incluso de lo que diga la fiscalía pensamos que este asunto no puede quedar

los responsables de este dislate tienen que asumir públicamente que se equivocaron y pedir perdón en definitiva asumir su responsabilidad consecuencia de determinadas decisiones ya digo que los ciudadanos vascos el conjunto de los ciudadanos vascos tenemos que pagar treinta millónes de euros esto por lo tanto no puede quedar así por eso pido el voto a todos los partidos políticos para que apoyen